lanean ari gara eta lanean jarraituko dugu hacemos lo que décimos y décimos lo que hacemos la brújula en nuestra actividad política diaria son las personas sus necesidades y el trabajo para mejorar las condiciones de vida de vascos

tenemos claro que estos no son los presupuestos que necesita este país tenemos claro que estos no son nuestros presupuestos pero hemos visto la posibilidad de mejorarlos

con plena determinación por todo ello hoy les anuncio que euskal herria bildu no va a presentar enmienda a la totalidad a los presupuestos de dos mil veintidós como muestra de nuestra voluntad sincera

eta ulermena agradezco la decisión del grupo parlamentario euskal herria bildu de no interponer enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos del gobierno

la importancia de la negociación y el diálogo presupuestario que hemos mantenido somos conscientes de que el gobierno tiene una mayoría parlamentaria pero siempre he manifestado nuestra disposición a ampliar los acuerdos para unas cuentas que tienen una importancia estratégica para la reactivación de la actividad económica la generación de oportunidades de empleo y la garantía de la cohesión social

superar las dificultades sanitarias económicas sociales y también emocionales producidas por la pandemia se abre ahora un proceso de negociación de enmiendas parciales que estamos convencidos mejorarán el proyecto presentado y ensancharán una base común a favor de las y de los ciudadanos de nuestro país

aprobó la ley de vivienda impulsada por los socialistas vascos

un hito para la historia de este país que produjo un punto de inflexión en las políticas de vivienda dándole un carácter mucho más social

vivienda y transportes que usted lidera ha remitido a esta cámara el plan director de vivienda dos mil veintiuno dos mil veintitrés que se sustanciará en comisión mediante comunicación quizás es por mi paso por la administración pero es que soy una convencida de que la planificación pero sobre todo el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas es una herramienta fundamental para avanzar en este caso en materia de vivienda en el desarrollo de esa ley de vivienda

y que hoy guía el rumbo de esas políticas del departamento que usted lidera señor arriola el anterior plan director de vivienda dos mil dieciocho dos mil veinte incorporó por primera vez en su enfoque el espíritu de la ley el objetivo

la función social de la vivienda y el derecho subjetivo de la ciudadanía a ella mediante la promoción preferente del alquiler el impulso de la rehabilitación

o la utilización de los pisos vacíos ese plan director de vivienda supuso en primer lugar un impulso inequívoco a las políticas de alquiler al desarrollo de alojamientos dotacionales y a la movilización de viviendas

en segundo lugar ese plan director ha propiciado políticas dirigidas a una gestión más eficiente del parque de viviendas protegidas dando una vertiente social

en tercer lugar han mejorado los procedimientos de adjudicación y revisión de los requisitos de acceso a la vivienda protegida en cuarto lugar ha apostado por la rehabilitación por la accesibilidad por la eficiencia energética por unas viviendas

en lo que ha sido también un impulso de las políticas para la regeneración de los barrios más degradados en quinto lugar ha supuesto también una innovación en la puesta en marcha de otros modelos que se adecuen a las necesidades de la población especialmente en políticas dirigidas a los jóvenes

que les da la oportunidad de emanciparse y sin duda de desarrollar en euskadi su proyecto de vida

estrategia para dar una oportunidad al envejecimiento poblacional y a las personas mayores

esa colaboración institucional también es la parte clave del éxito de las políticas de vivienda a través precisamente de políticas transversales

un documento estratégico que resulta central a la hora de desarrollar la ley de vivienda aprobada en dos mil quince por este parlamento y también a la hora de abordar los retos de la vivienda en euskadi ante la próxima presentación del nuevo plan director de vivienda en comisión parlamentaria una vez finalizada la vigencia del anterior

al consejero cuál es la valoración que hace usted señor consejero sobre la ejecución del anterior plan de director de vivienda dos mil dieciocho dos mil veinte eskerrik asko

gracias señora presidenta señora san josé como usted ha señalado el plan director de vivienda dos mil dieciocho dos mil veinte

de la ley vasca de vivienda en dos mil quince en cuyo desarrollo estamos volcados

este plan ha contribuido con sus ciento cuatro acciones y una ejecución presupuestaria

a avanzar en hacer realidad los efectos de esta ley resultado de ello es que en su periodo de vigencia que ha finalizado en estos momentos el nivel de cumplimiento de los objetivos ha sido elevado a pesar

negativos de la pandemia que estamos viviendo que nos afectó con toda su crudeza en el año dos mil veinte el último año de vida útil del plan

como le decía a pesar de ello veintiuno de los treinta y cinco indicadores de evaluación han alcanzado

como sabe el principal problema de euskadi en materia de vivienda es la escasez de oferta y por eso nuestros esfuerzos se han centrado en activarla el parque de vivienda del alquiler protegido ha alcanzado

cifra que supera los objetivos fijados esto lo hemos hecho iniciando nuevas viviendas y alojamientos dotacionales mil novecientos setenta y siete en total

nuevas viviendas también hemos hecho hincapié en la movilización de la vivienda vacía del parque privado

captadas además hemos reconocido seis mil ciento treinta y siete solicitudes de derecho subjetivo a la vivienda

que ha beneficiado a mil novecientos tres jóvenes en dos mil veinte ha pasado de iniciativa piloto a programa estructural del gobierno

ha respondido a las necesidades más graves de nuestra sociedad

como en la cesión de viviendas al tercer sector para proyectos de inclusión social y el programa de alternativa habitacional ante desahucios en este capítulo es muy destacable la ingente labor social

en materia de rehabilitación hemos mejorado la accesibilidad

hemos rehabilitado treinta y cinco mil cuatrocientos trece viviendas

y hemos movilizado el sector con un más que relevante aporte a la economía cada euro gastado en rehabilitación ha generado treinta y siete euros este claro efecto multiplicador de las ayudas

con la nueva orden de ayudas a la rehabilitación y la llegada

finalmente reiterar que algo más de la mitad de los hogares que viven en euskadi en alquiler

cuentan con apoyo público directo o indirecto del gobierno vasco bien a través del propio parque público de alquiler

en las viviendas libres en definitiva creo que hemos cumplido con los objetivos marcados por el plan y además adaptándonos

hemos sido capaces de diseñar y llevar a cabo medidas extraordinarias de protección a las familias más vulnerables

ayudas extraordinarias y suspensiones de desahucios creo que hemos cumplido eskerrik asko arriola jauna

más en concreto las medidas que recoge este documento que le muestro plan de contingencia de uci cuidados críticos en osakidetza para hacer frente a la pandemia por el virus

ondorioz es decir más allá del acierto o del desacierto de las medidas concretas que se adoptan para hacer frente al virus lo cierto es que hay problemas que son estructurales y que dificultan que

de la crisis sanitaria a esto me refiero a estos problemas me refiero y estos problemas sí que son una responsabilidad

del gobierno me estoy refiriendo en concreto a la inversión insuficiente en la sanidad pública

que existe entre los trabajadores de la sanidad y a la sobrecarga sistemática del trabajo también en el ámbito sanitario si nos fijamos por ejemplo en la falta de inversión en la sanidad pública los presupuestos vascos deben garantizar que hay un gasto sanitario per cápita que sea adecuado

en la seguridad de los usuarios de las usuarias o de las pacientes

es una comunidad autónoma y el lehendakari lo repite a menudo también que ciertamente invierte más euros por habitante en salud pública pero también es verdad que si hablamos en términos relativos

está entre las que menos lo hacen la comisión europea en el reciente informe que ha publicado dice que el estado español destinó en dos mil diecisiete por ejemplo

mientras que la media de la unión europea este mismo año era del nueve coma ocho invertidos los números en euskadi es el cinco coma dos por ciento del pib es decir más euros sí pero muy por debajo a nivel

en cuanto a la temporalidad también hay que decir que paradójicamente en el sector público en euskadi donde se concentra una mayor eventualidad

ha tenido el triste honor de estar a la cabeza en el ranking nacional en este aspecto y las contrataciones además que se han dado para combatir la pandemia

resulta que han disparado la tasa de temporalidad hasta un nuevo máximo histórico un cuarenta y dos coma tres por ciento aquí en euskadi

del estado que es del treinta y uno coma seis por ciento según los datos del tercer trimestre de la encuesta epa que elabora el ine en resumidas cuentas

más allá de las medidas concretas específicas en manos del gobierno está que la sanidad pública en euskadi siga teniendo la calidad que en algún momento tuvo y que desde luego ofrecen

usted ha traído a colación en esta intervención porque sobre esas cuestiones ya hemos hablado hasta la saciedad plenos de control plenos ordinarios plenos de debate de política general estamos en el debate de presupuestos usted me preguntaba qué medidas a nivel hospitalario piensa implementar el gobierno vasco para hacer frente a la covid y yo le he enseñado

para las medidas a nivel hospitalario que contempla aspectos organizativos del plan de contingencia la elaboración de los escenarios de despliegue de camas uci recursos materiales y humanos

cuadro de mando diario del plan de contingencia de uci y evaluación del plan de contingencia uci

aurten baino ehun eta hirurogeita zortzi milioi gehiago gorrotxategi andrea es cierto que nos encontramos en una etapa de ascenso de la tasa de incidencia desde el doce de octubre

y es gracias a la vacunación las personas ingresadas en los hospitales son ciento setenta y nueve cuando hemos llegado a tener quinientos cincuenta

las cifras son altas y debemos actuar para que no aumenten ahora bien

tienen capacidad organizativa y profesional para hacer frente a situaciones de mayor presión y dificultad hemos administrado tres coma seis millónes de vacunas

del noventa por ciento cuenta ya con la pauta completa y en paralelo este mes hemos administrado la vacuna de la gripe a casi medio millón de personas

y a cinco mil en las uci en este momento nos encontramos en el escenario de cinco en la disposición de camas uci estamos adoptando decisiones preventivas duplicar los equipos de rastreo incrementar los puntos para citas diagnósticas

hemos planteado la conveniencia de regular el certificado covid de vacunación al gobierno español al tribunal superior de justicia del país vasco al consejo interterritorial del sistema de salud y ahora al tribunal supremo de forma que esta medida necesaria de protección de la salud pública cuente con las debidas garantías jurídicas hori dena

el mismo año euskadi a la cabeza de las comunidades autónomas de españa en delitos de odio

hace dos semanas hoy por tanto le preguntamos por el incremento de las manifestaciones de odio e intolerancia

manifestaciones que afectan a derechos y libertades a la integridad de las personas a la convivencia

partimos de datos públicos y preocupantes que son el reflejo de situaciones mucho más frecuentes que se viven todos los días en nuestras calles en dos mil veinte siempre

casi la mitad de esos delitos tuvieron una motivación racista una quinta parte homófoba el diez por ciento tuvieron que ver con la diversidad funcional de las personas

u orientación política algo que en el partido popular sabemos por desgracia muy de primera mano

odio o intolerancia con muy diversas manifestaciones y parece claro que sobran motivos de inquietud a medida que ganamos en capacidad para detectar el problema tenemos una fotografía más completa y menos aceptable de la realidad en lo que a odio se refiere euskadi

del odio fue sistemática y concienzuda durante décadas en euskadi

quienes lo promovieron y promueven nunca han reconocido lo ilegítimo e inhumano de tal actuación y la legitimación de ese odio parece hoy extender sus efectos en múltiples direcciones para atajar esta situación lo primero es reconocer el problema su gravedad y su alcance y aquí tenemos también la primera dificultad porque mientras

otras voces en su propio gobierno les contradicen desde la consejería de igualdad se ponía precisamente el acento en el incremento de la tolerancia

de este mismo mes lo cierto sin embargo lehendakari es que casi la mitad de esos cientos de delitos de odio cada año

racista o xenófoba y que su número va creciendo como usted sabe lamentablemente una realidad que no se cambia a golpe de encuesta desgraciadamente por eso le pregunto lehendakari
cómo valora el incremento de los delitos de odio y la intolerancia en nuestra tierra aquí en el país vasco eskerrik asko

eskerrik asko lehendakari jauna por supuesto que no pongo en duda que se denuncian solo faltaría

que tenemos en nuestra tierra y que no se puede esconder la cabeza como el avestruz porque hablando de cabezas estamos a la cabeza en xenofobia en homofobia en persecución de ideas políticas la peor como le decía antes una de las peores situaciones del conjunto de españa lehendakari no lo digo yo lo dicen también los datos lo dice su vicelehendakari lo dice la propia ertzaintza incremento del siete por ciento en el año dos mil once por supuesto la inmensa

somos personas tolerantes y respetuosas y nuestro grupo

otras instituciones que han vuelto a dar la voz de alarma e hizo bien hicieron bien el señor erkoreka hizo lo correcto en dar esa voz

no nos podemos dar satisfechos con las encuestas hace falta una posición

sólida del gobierno menos contradicciones del propio gobierno el señor erkoreka o la señora artolazabal

y sin duda alguna el caldo de cultivo del odio es lo que hay que erradicar que ahí estamos imagino todos juntos y sin duda alguna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz le puedo asegurar

en la que el componente fundamental es la xenofobia tal y como usted afirma este mes se ha presentado el barómetro dos mil veintiuno

y la conclusión es clara y le cito el índice de tolerancia de la población vasca hacia las personas de origen extranjero

la sociedad vasca ha respondido a la crisis sanitaria económica y psicosocial provocada por la covid diecinueve con una mayor tolerancia pudiendo más la solidaridad

registrado más incidentes en el ámbito policial y eso no es contradictorio el informe de incidentes de odio dos mil veinte que elabora el departamento de seguridad

es claro y le leo literalmente lo que concluye este informe y dice así el motivo del incremento se debe a la experiencia de años anteriores en la recogida y registro de datos el trabajo conjunto entre la ertzaintza y la universidad

ha permitido mejorar la detección y centralización de la información relativa a este tipo de incidentes cuanta más conciencia más denuncia y esto es lo positivo eso no quiere decir que haya más casos

y registro de los incidentes esta misma conclusión se extrae señor iturgaiz del análisis del informe de la evolución de los delitos de odio de españa dos mil veinte publicado por el ministerio de interior y este informe pública una

metodológica relacionada con los datos del país vasco en los que especifica y leo literalmente no es posible relacionar directamente

con un aumento de los hechos acaecidos ya que unido a la continuidad de la formación se ha reforzado uno de los niveles de análisis cualitativos

esto es lo que dice el informe de la evolución de los delitos de odio de españa dos mil veinte publicado por el ministerio de interior

es cierto que las denuncias de delitos de odio en euskadi han aumentado pero se debe a que estamos logrando aflorar este tipo de delitos en mayor medida gracias a la labor de la ertzaintza y las policías locales cada vez se detectan y se denuncian más delitos le ofreceré

según el sociómetro vasco solo un ocho por ciento de la población considera que su pueblo o ciudad no es un lugar seguro mientras el noventa por ciento

seguro mi valoración por lo tanto es que el camino emprendido de mayor concienciación social y mejora de la eficacia del servicio de detección y registro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

hace aproximadamente un mes cuando en europa ya empezaban a sonar las alarmas de una sexta ola de contagio por covid la consejera sagardui

una vez más su gobierno ha pecado de imprevisión y de improvisación

es el recurso al certificado covid como herramienta para frenar los contagios no donde parece que se están produciendo en los colegios sino en los locales de ocio nocturno

a pesar del frenazo del tribunal superior de justicia del país vasco a sus pretensiones

por el certificado covid para el control de acceso de personas no vacunadas a locales de ocio nocturno restaurantes y eventos varios

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez me voy a quedar de momento en intentar despejar una cuestión que

de incongruencia por lo que usted ha dicho porque afirma usted en la justificación de su pregunta y aquí lo ha mencionado

en el último pleno de control esto no es cierto

le voy a leer lo que le dijo la consejera en dicho pleno

seguiremos atentos a la evolución de la pandemia alertas por si fuera necesario adoptar medidas preventivas superiores a las que tenemos en estos momentos porque las tenemos

además de criticar el escaso trabajo realizado por su equipo para defender la implantación del certificado covid tan solo once folios y mal argumentados los magistrados del tribunal superior de justicia del país vasco sentenciaron que su implantación vulnera derechos fundamentales de las personas igualdad intimidad

actualmente estamos en el noventa por ciento de personas vacunadas mayores de doce años usted mismo lo ha dicho según sus propios datos y después de escuchar al consejero bildarratz parece que el repunte de contagios es especialmente significativo

colectivo aun sin vacunar chavales a los que no se ve en los locales de ocio nocturno pero que sí podemos ver en los restaurantes sin embargo una vez más usted pone el foco de las culpas en la hostelería una obsesión además durante los meses de pandemia vuelve a señalar como espacios donde la pandemia crece dice que por la relajación de las personas relajación que por lo visto solo se produce en bares y restaurantes no en manifestaciones abertzales ferias o colegios

sean quienes comprueben los certificados covid y los datos que en ellos figuran

una clarísima violación de la ley de protección de datos que usted defiende argumentando que el consejo interterritorial no ha tomado decisiones para el conjunto del estado

desde el minuto uno usted ha convertido en seña de identidad su reivindicación de la gestión autonómica de la pandemia global

en repetidas ocasiones sin embargo ahora pide colaboración y coordinación todos a una después de meses en los que usted ha sido firme defensor de la gestión autonómica si pretende que la vacunación sea obligatoria dígalo no es de recibo que imponga la vacunación por la puerta de atrás

deberían explicarnos por ejemplo qué está sucediendo para que en el país vasco se doble la incidencia al conjunto de españa será por la afición de los niños vascos menores de doce años a frecuentar locales de ocio nocturno y restaurantes

anuncios de tiempos peores muchos empresarios que no saben a qué atenerse muchos negocios cuya supervivencia pasa por unas fiestas navideñas lo más normales posibles

la decisión del tribunal superior de justicia del país vasco para no autorizar el pasaporte covid dos días después el veinticuatro de noviembre sí lo hizo

llevo tres plenos de control consecutivos advirtiéndole de que no hace usted más que un ejercicio de exageración

de sacar las frases de contexto de manipulación de lo que uno dice y no dice en fin siga usted por la misma línea en todo caso yo

le reitero la misma idea seguimiento diario y adopción de las medidas que sean necesarias eso sí siempre con la máxima seguridad jurídica señora martínez por eso solicitamos desde un principio el estado de alarma nosotros

yo por eso solicitamos la prórroga del estado de alarma nosotros yo señora martínez por eso solicitamos la adecuación de la ley de salud pública estatal yo señora martínez o en su caso la aprobación de una nueva ley ante el enredo

contradictorias a las que hemos asistido y estamos asistiendo las autoridades sanitarias aconsejaron al gobierno el certificado covid para el control de acceso de personas

nuestra única razón es preservar la salud y la vida de las personas en medio mundo se exige el certificado covid por esta razón hemos propuesto esta medida y a pesar de estar aplicándose con éxito en nuestro entorno el tribunal de justicia del país vasco no lo autorizó

después de comprobar que ni el gobierno español ni el consejo interterritorial de sanidad asumen garantizar la cobertura jurídica hemos decidido presentar recurso de casación ante el tribunal supremo nuestra razón es responder con responsabilidad

la implantación del certificado covid es una medida que se extiende en todo el mundo en europa y en varias comunidades autónomas es una medida adecuada oportuna y proporcionada para reforzar la eficacia de la vacuna no supone limitación alguna ni en la movilidad ni en la actividad social

un acuerdo que determine para el conjunto del estado la regulación del uso del llamado pasaporte covid junto a ello hemos planteado medidas adicionales

acelerar la llegada de la vacuna pediátrica para su administración a menores de doce años señora martínez lo hemos pedido nosotros la vacuna es la herramienta más eficaz

una persona no vacunada puede contagiar a las demás las evidencias científicas internacionales demuestran que la posibilidad de que una persona no vacunada sea hospitalizada es cinco veces superior el certificado covid refuerza el proceso de vacunación y lo está haciendo

quien no se vacuna ha de entender que la sociedad debe protegerse del riesgo que representa su decisión vacunarse es la medida más eficaz para salvar vidas y proteger
la salud la propia y la de los demás eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera

señora consejera el sector de máquina herramienta es un sector clave en la economía vasca y una de nuestras señas de identidad según datos del propio gobierno vasco en dos mil dieciocho

se construye aquí en euskadi y españa es la tercera del mundo además tenemos la bienal española de máquina herramienta que es una de las ferias industriales más importantes del mundo y la más importante de españa y que volverá en junio de dos mil veintidós

actualmente el sector atraviesa un momento difícil como consecuencia de la pandemia es un sector que a su vez depende en parte de la salud de otros sectores

o la automoción el año pasado fue un año además muy negativo para este sector

y las exportaciones un veintidós por ciento a pesar del crecimiento estimado para este año en torno al quince por ciento no se recuperará el nivel prepandemia por lo pronto hasta dos mil veintidós y por lo tanto el sector va a seguir necesitando ayuda para volver al nivel prepandemia y en este escenario el gobierno vasco reduce de dos millónes

por eso señora consejera nos puede explicar por qué no se mantiene el importe en euskadi cuáles son los criterios que ha seguido sido usted o su departamento para una reducción tan importante gracias

en marcha por primera vez en dos mil dieciséis a la vista de las necesidades de nuestras pymes de modernización

procesos productivos de eficiencia energética y demás además de modernizar el equipamiento pretendíamos que nuestras empresas pudieran alcanzar

desde spri desde la agencia vasca de desarrollo empresarial se pusieron en marcha año dieciséis y año diecisiete este programa de renove

posteriormente en el año dos mil veinte como consecuencia de la crisis económica surgida tras la crisis de la pandemia no solo el sector de la máquina herramienta sufría sino todos los demás también

dotado con cinco millónes de euros al que se presentaron noventa proyectos dado que se puso en marcha se publicó en septiembre el catorce de septiembre y existían o se ponían en marcha doce meses para poder ejecutar esos presupuestos de los cinco millónes y el cincuenta por ciento en el momento de la concesión eran dotados a las empresas y a los proyectos adjudicatarios

lo que puede restar de esos proyectos de esa convocatoria de cinco millónes que puede llegar al dos mil veintidós no obstante además de este programa existe otro que usted conocerá muy bien que se denomina renueve industria cuatro punto cero en el que además de la maquinaria pretendemos renovar

que es lo que realmente haría falta pero lo que es evidente es que estos números que acabamos de ver lo que ponen de manifiesto son las prioridades de su gobierno y deja en evidencia que mientras casi se cargan el renove de máquina herramienta

comprobamos que los presupuestos que usted ha presentado incluyen un incremento por ciento nada más y nada menos de presupuesto para e i te be batiendo el record de ser la televisión más cara por habitante o los quinientos cincuenta y cuatro millónes que llevamos gastados en cuatro años en impulsar el euskera invertir en el sector de máquina herramienta también es invertir en euskadi es invertir en un sector que genera riqueza y empleo pero que necesita ayuda para salir de la crisis este año no nos va a bastar solamente con ese remanente del programa

puesto al servicio de un proyecto político nacionalista cambie de prioridades y cambie de objetivo para no

que somos mejores gestores que los demás cuando luego realmente los presupuestos o no los ejecutamos

o los reducimos muchas gracias eskerrik asko gil jauna tapia andrea señor gil en este momento
prioritario para este gobierno pero para este país también la digitalización la automatización y desde luego el salto cualitativo de nuestro tejido productivo de ahí que el programa no se llama en este momento

que en el año dos mil diecinueve dotado con cuatro millónes de euros tuvo doscientos treinta y cuatro proyectos presentados de los cuales se aprobaron noventa y ocho

tiene el veintiuno ciento ochenta y nueve proyectos presentados que se están analizando en este momento con una dotación de cinco millónes ese es el camino que tenemos que continuar y eso es lo que nos dice el sector en el estado español es la primera vez primera vez que se dota un programa de estas características y se saca la convocatoria porque ha habido una dotación que no se ejecutó de cincuenta millónes de euros y que permite que se pueda complementar lo que se está haciendo desde euskadi y desde luego señor gil si ustedes estaban tan preocupados por este tema

influenciar en el estado para que ese presupuesto que este año desde luego haya salido a convocatoria pública por una enmienda del partido nacionalista vasco por cierto no la han conseguido establecer ustedes dónde han estado hasta ahora nosotros continuamos con la modernización del tejido productivo

no solo maquinaria sino todo el software y todos los sistemas automáticos y electrónicos que son necesarios para que eso sea una realidad eskerrik asko

baitan datoz baina orain beste otra vuelta de tuerca dator

izango litzateke bigarrenik ingurumen ikuspegitik la ocupación de terreno por parte de este tipo de actuaciones desde luego decíamos de líneas de más de ciento cincuenta kilómetros muy alejadas de los puntos de consumo y desde luego muy alejadas de los puntos de evacuación de los puntos de generación consideramos que ocupan un terreno que no está justificado y que es perfectamente evitable con otras alternativas por tanto es una prioridad

es realmente necesario construir esas nuevas líneas necesitamos construir esas nuevas líneas tal como se han planteado o existen otras alternativas tal como lo decíamos y además nos está limitando absolutamente y tenemos que reforzar nuestras propias líneas las que ya existen si hace falta incrementar su potencia pero no entendemos que haga falta en este caso construir

con las líneas que tenemos el refuerzo de los puntos de conexión y el refuerzo de la potencia si hiciera falta

sería suficiente por tanto entendemos que desde ese punto de vista también lo tenemos que tener la planificación

creemos que tenemos que evaluar todas las circunstancias que lleven a tenerlas en cuenta considerar todas las comunidades afectadas y desde luego buscar la mejor de las soluciones

desde el punto de vista ambiental insisto creemos que la tramitación de las líneas que se están haciendo en este momento va en contra de esos criterios básicos de cercanía de producción a cercanía de distribución y que los puntos de evacuación también se encuentren los más cercanos posibles

acuerdos entre ellos los acuerdos para reducir las emisiones de metano y la reducción en la financiación pública en combustibles fósiles el gobierno vasco en su proyecto

tres ejercicios para seguir explotando hidrocarburos y sigue participando en sociedades que explotan el gas como bahía de bizkaia itxasgas o enagas transportes del norte hasta cuándo va a seguir el gobierno vasco invirtiendo dinero público en estas sociedades que van en contra de los objetivos

y a los legislativos y también a todos los agentes políticos y sociales y dentro de la imperfección del acuerdo decíamos desde luego como valoración del gobierno que es un acuerdo histórico que es un acuerdo que implica a muchos estados y a muchos agentes

lleva la implementación a la acción y que es un acuerdo solidario solidario con esos países más vulnerables pero esa vulnerabilidad no nace y termina con que les pongamos recursos económicos sino que podamos desde luego considerarlos de otra forma

real y sincera si somos capaces de no desear en sus terrenos lo que no deseamos en los nuestros de nada sirve que mantengamos nuestro suelo y nuestro terreno intacto si estamos después

el dinero que ponemos en ese fondo para que los países más pobres sigan actuando porque necesitamos lo que ellos hacen por tanto vamos a trabajar desde la solidaridad desde la ecología y desde lo que dice la cumbre

pero vamos a euskadi en euskadi hemos asumido los compromisos de la cumbre

para que puedan ser una realidad pero el gas sigue siendo una energía de transición

económicos y nuestra sociedad todavía depende al menos en un tercio del gas y tenemos que trabajar por sustituirlo por hidrógeno o por biogás pero entre tanto la propia

bueno pues ha ido argelia a garantizar el suministro para toda la población y el suministro para toda la población también pasa por esa instalación que tenemos en bilbao en

para que los metaneros puedan llegar a euskadi y puedan traer la energía que necesitamos por tanto la transición lo decía el señor otero hay que hacerla planificada pensada y bien ordenada de un día para otro las cosas no se pueden hacer nuestro compromiso es absoluto

que tiene que ser una transición ordenada y justa eskerrik asko

necesario en estos momentos y también de transición pero lo es porque su gobierno así como otros tantos no iniciaron la transición en los años noventa llevan estirando el negocio del gas hasta que el acuerdo de parís

si hubiesemos invertido en renovables desde los años noventa hoy euskadi estaría probablemente muy cerca de ser soberana energéticamente y no dependiente del gas las renovables sí pero de manera ordenada y planificada como usted decía porque el pts de energías renovables no se le espera hasta el dos mil veintitrés

protegidos por cierto elemento que también se permitirá a través de la ley de patrimonio

ayer y respecto al hidrógeno nos parece muy bien la transición del sector gasístico al hidrógeno pero lo que no vemos es que vuelvan a ir de la mano del gobierno las inversiones y la transición de determinadas empresas del oligopolio de los hidrocarburos

oligopolio del hidrógeno donde sí creemos que debería ir el dinero público es en avanzar en la soberanía energética para en este caso desenchufarnos del oligopolio

en este sentido para crear una empresa pública de energía de cara a la comercialización de energía

combustibles fósiles recientemente además una multinacional

endesa concretamente que abandonará todos sus activos de gas incluidos las plantas de ciclo combinado

en euskadi y si en relación con esto existe alguna fecha eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

siento que estamos en el día de la marmota discutiendo siempre sobre lo mismo pero la fecha es la que marca la cumbre de glasgow evidentemente dos mil cincuenta para la descarbonización absoluta de toda la economía

energías renovables eficiencia energética y almacenamiento esas son las tres variables con las que tenemos que trabajar pero entre tanto eso de la soberanía energética pues me encantaría poderlo compartir pero es que además

hay que ser realista y hay que ser realista en este momento estamos absolutamente conectados a otros lugares gracias a ello tenemos la energía suficiente para poder seguir sobreviviendo y desde luego tenemos que ser conscientes que no es que euskadi haya decidido hacer una apuesta por el gas como energía de transición es que lo hace todo el mundo perdón

realistas luego vamos a trabajar en esa descarbonización y desde luego desde la aprobación de la ley de cambio climático

claras no obstante insisto vamos a seguir de forma ordenada y de forma planificada esa posible transición y esa descarbonización necesaria

conseguir los objetivos planteados todo va a ser necesario instalaciones de mayor dimensión y de menor dimensión y desde el punto de vista ambiental con todas las garantías

lugar no se pueden establecer ese tipo de instalaciones no se hará pero desde luego allí donde se pueda vamos a tener que trabajar por que sea así vamos a hacer todo lo necesario

y solidaria y desde la solidaridad de no
tratar de que el vecino haga lo que nosotros no hacemos eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabigarren puntua interpelazioa

cuando hablamos de predoctorales hablamos de trabajadoras que están haciendo una aportación ingente a la sociedad gracias a su proceso y proyecto de investigación

además el gobierno vasco se comprometió hace dos años a subir el sueldo de estas trabajadoras aquellas que perciben la beca del gobierno vasco ikertzaileek

es decir a los investigadores postdoctorales que perciben la ayuda margarita salas

cosa que incumple la ley de ciencia y tecnología en su artículo veintidós y también el convenio de la upv del personal docente e investigador el cual marca para estos trabajadores

euros brutos al año pero además ehu no ha sacado la convocatoria para la especialización de doctores que saca anualmente en la cual se cumple el convenio del pdi como bien ha remarcado el colectivo de profesores investigadores postdoctorales

lanari esker contamos ya con más de veintiuno mil personas que se dedican total o parcialmente

esto supone que dos de cada cien trabajadores en euskadi se dedican a actividades

muy revelador de la apuesta el compromiso y la implicación de nuestro gobierno con la ciencia pero no es el único euskadi da ikerketa eta garapen ekintzetan

hogeita hamarean baino gehiagon parte hartzen dute y todo esto no se podría hacer si la contribución fundamental del personal investigador su potencial y su dedicación por tanto el personal investigador se configura como la pieza clave de estos resultados y por ello seguimos formando una cantera

e investigadoras cada año aumenta el número de estudiantes que han logrado su doctorado un hecho que sin duda contribuirá a que sigamos siendo tan relevantes en el campo de la investigación a nivel internacional en dos mil diecinueve se han doctorado cuatrocientos cincuenta personas en las tres universidades vascas un diecisiete

colaboran a la hora de publicar los resultados de la investigación con los principales países productores de ciencia a nivel mundial como estados unidos alemania reino unido francia e italia

decir que los programas de equipamiento científico de pequeño medio y gran envergadura han sido impulsados constatando una inversión económica creciente durante estos años tanto en grandes infraestructuras singulares como la anunciada en torno al microscopio criogénico u otros planes de dotación

las mejoras que se han realizado en las últimas convocatorias de personal investigador para reforzar los programas predoctorales postdoctorales y de movilidad de personal investigador doctor además en el próximo ejercicio se incrementa

a la financiación de los programas de formación de investigadores estos programas incrementarán un cinco por ciento el número de beneficiarios en el programa predoctoral y un siete coma cinco por ciento en el programa posdoctoral podré darle mayor detalle

hache hogei hogei ikerketa proiektuetan horizon dos mil veinte programa egungo horizon europe

ezin dut ulertu nola esan dezakegun que el personal investigador es pieza clave y que

relevantes en el ámbito internacional pues también seremos relevantes en el ámbito internacional en lo precario porque estas personas no llegan a cobrar mil euros orduan

de excelencia el mayor presupuesto con el que hemos contado en nuestra historia lo que representa un incremento del seis coma tres con respecto al año anterior

infraestructuras científicas de investigación un dieciséis coma siete por ciento alcanzando los ocho coma cinco millónes de euros

para el ejercicio dos mil veintidós eso también debe considerarse mejoras de las condiciones laborales de nuestros investigadores zuk lan baldintzez hitz egin duzu nik

recogió un incremento promedio cercano

diez por ciento en el salario que percibe el personal investigador a través de estos contratos predoctorales

con discapacidad en la convocatoria dos mil veintiuno veintidós se incorpora una nueva línea de investigación en educación con el objetivo de potenciar la investigación en una serie de líneas estratégicas

con respecto a las dos convocatorias anteriores para la formación de investigadores e investigadoras se aumenta un cinco por ciento

predoctorales debe ponerse en valor también el plan formativo específico recogido en los programas de doctorado y las estancias de investigación en el extranjero que les permite obtener

se aporta al personal beneficiario una ayuda complementaria

durante los dos primeros años que reduce el impacto económico del desplazamiento

en la convocatoria veintiuno veintidós se han incrementado además las retribuciones un seis por ciento para el personal investigador en el tercer y último año del programa

se aumenta además un siete coma cinco por ciento el número de nuevas ayudas de la convocatoria en lo relativo

desde la convocatoria de dos mil diecinueve se ha incorporado una modalidad para favorecer la movilidad de personal investigador junior

a percibir por los beneficiarios para la realización de la estancia de investigación bestalde

decía que uno de cada cinco alumnos y alumnas entre cuarto de primaria y cuarto de la eso habían recibido algún tipo de

también los datos de ikusmira nos dicen también que en dos mil dieciocho al menos un veinte por ciento del alumnado de primaria reconocía haber sufrido algún tipo de maltrato eta gero ere bai

ikerketa eta datuak ere plazaratu dira en el plan marco para el desarrollo de una escuela inclusiva del año dos mil diecinueve dos mil veintidós

públicos para el curso anterior zuek emandako datuen arabera hori

programa horrek daukan ahuleziak ere ikusten ditugu no todo el colegio trabaja en

de los medios que se tiene y también está condicionado a esos recursos y que además no se da en el conjunto del sistema

de dar la excusa para hacer esta pregunta no ha sido otra que un gran triunfo

que hemos obtenido como sociedad que ha sido la aprobación de la ley orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia contra toda forma de violencia

senatuan además no queremos entrar ahora por si me adelanto porque seguramente me voy a quedar sin tiempo me adelanto no

de la competencia sino de lo que vamos a hacer en euskadi para hacer frente a los abusos en la escuela

lo diga la ley o no lo diga la ley una figura de coordinación de bienestar en los centros públicos y concertados de euskadi o no si lo quiere hacer en base a su programa de gobierno

en base a la futura ley de educación de euskadi que usted siempre dice que hay que acordarla entre todos y entre todas nosotros estamos

un buen espacio para hacerlo pero no veo mucha voluntad por su parte para hacerlo y lo lamento por tanto la pregunta se la reitero

como desde lo social en la lucha contra la violencia en la infancia y a la promoción de los derechos de los niños niñas y adolescentes hezkuntzari buruzko

edo digitalki edo beste era batean ematen diren en este contexto si bien es cierto que la ley orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia

independientemente de su titularidad deberán tener un coordinador o coordinadora de bienestar y protección del alumnado que actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del centro sus funciones

existentes en nuestra estructura laburbilduz hauek dira funtzio adierazgarrienetako batzuk

las funciones del coordinador de bienestar se desarrollan preferentemente por el responsable de igualdad o el de coeducación del centro en los centros

en la estrategia bizikasi promovida por el departamento de educación

de manera explícita en las instrucciones de inicio de curso trasladadas a todos todos los centros educativos en la resolución

señores consejeros señores parlamentarios pues

y es que gracias a la ubicación geográfica que tiene esta tierra en el eje atlántico es decir

donde nos ubicamos y encima tenemos la suerte de tener buenas

la conexión de mercancías de ese eje pero qué pasa

aunque tengamos tres aeropuertos tenemos dos puertos de interés general quince puertos que son ya de competencia de este gobierno tenemos un tren de cercanías tenemos trenbide sarea que gestiona

y también tenemos la futura llegada de la alta velocidad al país vasco con un tráfico mixto es decir de mercancías y de pasajeros

con esas infraestructuras llegando no llegando gestionándolas pero realmente

no ha habido ninguna estrategia de dar valor a esas infraestructuras y empiezo por tierra mar y aire vamos a empezar por tierra

de lo que es la alta velocidad en el país vasco cómo va a llegar la alta velocidad

bidegorri que acabamos de firmar o que vamos a firmar

de zaratamo cantalojas pero que hay que hacer unas gestiones administrativas bueno vale es decir no tenemos nada poco

poco lo siguiente vamos a hablar del mar puerto de bilbao

lo que se ha hecho desde el gobierno vasco es darle prioridad al puerto de bilbao

nos está apagando forma parte de la estrategia que ha seguido el gobierno vasco

tenemos los quince puertos que son de nuestra competencia y por ejemplo el de ondarroa falta de calado un millón

no tiene dique de contención y si lo tiene se lo vamos a poner tarde porque ya llevamos veinte años sin dique de contención mal vamos tarde y si hablamos de

tenemos proyecto durango del tren de durango que lo que dice

es creamos mesas de diálogo anunciamos que vamos a reunirnos anunciamos que tenemos intención de avanzar asumimos el reto trabajaremos por ello y para

quiero decir con respecto a infraestructuras el departamento que lleva el señor arriola no siempre lo ha llevado usted pues

a culminar a colmatar lo que sería una conexión

que gracias que tenemos todas esas infraestructuras pero habrá que hacer algo para ponerlas en relevancia en el eje atlántico si nosotros no somos capaces de dar valor a lo que tenemos mediante las competencias que aquí se ostentan poco vamos a ser competitivos a nivel internacional esto funciona así si nosotros no ponemos en valor si nosotros no invertimos en mantenimiento en creación de conexiones punteras con las grandes infraestructuras del país vasco al final nos quedamos

y ahora que le toca a usted señor arriola me gustaría saber cuál es su estrategia para poner en valor

para que seamos punteros a nivel internacional en ese eje atlántico

gracias presidenta señora larrea antes de nada me gustaría aclarar una cuestión el nombre

nuestro departamento no es departamento de infraestructuras vivienda y transporte

de su interpelación sino departamento de planificación territorial

dejar constancia del nombre real del departamento por otra parte además del texto de la pregunta también tengo la costumbre de leerme la justificación que acompaña a las interpelaciones y la suya es realmente curiosa

tres aeropuertos dos puertos de interés general y tres estaciones

infraestructuras de interés general cuya gestión como usted bien conoce no es competencia de este gobierno o al menos a día de hoy sino de la administración general del estado que no es el caso podría haber elegido otros ejemplos en los que sí somos competentes pero no ha sido así le ha faltado

de competencia municipal a propósito los puertos autonómicos no son competencia de mi departamento compete al departamento de desarrollo económico también dice en la justificación de la interpelación que vamos a contar en breve con tres estaciones del ave lleva usted un año asegurando que no vamos a ver estas estaciones en décadas y hoy sorpresivamente nos cuenta que vamos a disponer de ellas enseguida

y por cierto las estaciones vascas a las que va a llegar el tren de alta velocidad no van a ser tres sino cuatro vitoria gasteiz san sebastián bilbao

en primer lugar y para conocer en qué escenario nos movemos debemos de tener en cuenta la distribución competencial

administraciones desde la estatal hasta la municipal en cada una de las áreas que integran la movilidad

por el que se establece la estructura orgánica y funcional del departamento de planificación territorial vivienda y transportes en su artículo catorce

encomendados el diseño y desarrollo de los instrumentos dirigidos a la ordenación concertación y coordinación en esta materia así como la formulación de las políticas de planificación de las infraestructuras de transporte introducido este aspecto queda fuera de toda duda

debe hacerse mediante la definición de una disposición normativa

que determine el ámbito normativo básico respecto de los principios y objetivos a los que debe tenderse de forma general e integrada

está elaborando el anteproyecto está redactado y se encuentra en su fase administrativa final

a nuestras previsiones será aprobado por el consejo de gobierno

para inmediatamente después comenzar su tramitación parlamentaria el citado borrador ha podido tener acceso en las distintas fases a través de la web del gobierno vasco ya establece cuáles son los principios y objetivos de nuestra política

en concreto establece el marco para impulsar la movilidad sostenible en euskadi basada en la movilidad activa

la interoperabilidad de los títulos de transporte público en un sistema integrado intermodal la implementación

de movilidad sostenible desde el urbanismo en los municipios y la promoción de transporte ferroviario el impulso de la movilidad sostenible es un objetivo ineludible más si tenemos en cuenta que en dos mil diecinueve se emitieron en euskadi dieciocho coma cinco millónes de toneladas de gases de efecto invernadero

correspondieron al transporte en ese mismo año euskadi registró cuatrocientos cincuenta y ocho coma seis turismos

con un incremento del parque de vehículos del uno por ciento en el que el ochenta y seis por ciento son turismos camiones y furgonetas la ley de movilidad sostenible

y establece también obligaciones concretas a todas las administraciones entre ellas

y en consonancia con los jerárquicamente superiores a efectos de aunar todos los esfuerzos de nuestra comunidad autónoma en una misma

además el anteproyecto pretende apuntalar los derechos a la información de la ciudadanía en general y apuesta por un sistema de transporte integrado eficiente seguro e inclusivo y respetuoso con el medio ambiente y la salud de las personas

abriendo a las diputaciones forales y ayuntamientos la posibilidad de utilizar esta herramienta

política económica para contribuir a la movilidad sostenible este marco legal será acompañado de la elaboración de un plan de movilidad sostenible autonómico que establecerá las directrices para garantizar que los sistemas de transporte de euskadi se ajustan a las necesidades económicas

del territorio la elaboración de este plan contará con participación pública y unas herramientas para su seguimiento de acceso público

verificar el cumplimiento de los objetivos marcados por la ley a través de acciones concretas y cuantificables este es

que está acompañado de actuaciones en materia de infraestructuras unas actuaciones dirigidas a potenciar la intermodalidad del transporte de personas y mercancías

y de centros logísticos integrada y coordinada impulsar

e incentivar la competitividad de nuestro tejido económico a ello destinamos un importante volumen de recursos anuales que en el próximo ejercicio a trescientos sesenta y cinco coma siete millónes de euros esto nos va a permitir acometer las actuaciones definidas

y seguir avanzando en la modernización del sistema de transportes de euskadi ejemplo de ello son tanto el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias previstas que van a tener

como la implementación y ampliación de la red tranviaria y del bus eléctrico inteligente en donostia san sebastián y vitoria gasteiz

vasca tanto en el marco de nuestras competencias directas como a través de las fórmulas de cooperación

que favorezcan la ejecución de la línea de alta velocidad como ve señora larrea la estrategia del departamento en materia de infraestructuras y transporte se centra básicamente en el impulso a la

y la construcción de infraestructuras que faciliten en la práctica la consecución de estos objetivos

gracias pues mire señor arriola la estrategia de su departamento está clara

pero a mí lo que me falta son hechos llevamos años con el tema de la movilidad sostenible llevamos mucho tiempo con grandes infraestructuras la creación de grandes infraestructuras que vayan

beneficio a euskadi pero dónde están claro es que yo no vengo aquí a preguntarle qué es lo que tiene que hacer qué es lo va a hacer sabe lo que pasa que es que al final años perdemos tiempo perdemos generaciones y parece que no estamos llegando a conclusiones y el problema es que cuando yo le pregunto a usted cuál es su estrategia

lo que se hacía antes lo mismo pero qué pasa que en treinta años no hemos llegado a la finalidad de esa estrategia a culminar esa estrategia yo entiendo que cada vez hay que ir generando estrategias nuevas una vez que se hayan colmatado las que ya habíamos

pero cuál es el problema que se sienten satisfechos por lo que van haciendo planifican

pero cuál es la realidad de lo que tenemos en estos momentos

se han dado avances en prensa se han anunciado reuniones

de movilidad sostenible vale se habla usted solo quiere hablar de las competencias que usted tiene quiere hablar de las competencias municipales

forales no quiere hablar del resto pero también tiene usted que coordinar también tendrá usted que traer tendrá que ser capaz de negociar y de coordinar

los socios de gobierno que sustentan el gobierno en el que usted está tienen

de que tienen buena entrada en madrid pues no

durante muchísimos años una cierta fobia a poner relevancia

de interés general que teníamos aquí y que nos ha dado como así como no sé un poquito de cosa

que nos empobrecemos que no sacamos la cabeza no sacamos la cabeza porque además nos centramos en discursos

a quiénes nos estamos dirigiendo si nos dirigimos a la sociedad ustedes se creen

le entienden los ciudadanos de euskadi los ciudadanos de euskadi lo que ven son leen la prensa

van al puerto y no hay nada van a ezkio

y no hay nada esto es lo que pasa esta es la realidad y yo entiendo que usted quiera y tenga que viene aquí y viene a explicarnos lo que hace su departamento y viene a explicarnos

da igual porque lo que importa son los hechos y de esos hay pocos gracias eskerrik asko larrea andrea

señora larrea yo vengo aquí a explicar lo que usted me pregunta ni más ni menos

como consecuencia de esta interpelación y que ya la tendrá seguramente bueno ya la veremos próximamente creo que

y de los instrumentos en los que nos apoyamos para llevarlos a cabo pero puedo ser

trabajamos para lograr en euskadi un sistema de transporte público sostenible eficiente accesible para toda la ciudadanía porque creemos que todas las personas en especial aquellas con menos recursos tienen derecho a disponer de un transporte público de calidad

y en este sentido estamos realizando un importante esfuerzo para impulsar tanto un marco normativo adecuado como la construcción de nuevas y mejores infraestructuras ferroviarias trenes tranvías metro etcétera tanto de pasajeros como de mercancías y estamos convencidos de que esta legislatura va a ser fructífera en este terreno

de desgranar los proyectos en los que estamos inmersos porque cada vez que puede su partido

saca a relucir el tema del transporte aéreo en euskadi

los tres aeropuertos vascos no son competencia de este gobierno son competencia del gobierno de españa que los gestiona a través

y aún así nuestro departamento está muy presente y participa de forma activa en el impulso de las terminales vascas especialmente

porque estamos integrados en sus sociedades de promoción y de hecho en los presupuestos del año veintidós se recogen

destinada a la sociedad de promoción ortzibia para el aeropuerto de hondarribia

para la sociedad de promoción del aeropuerto de foronda cumpliendo

en el seno del consejo de administración de via también colaboramos con la cámara de comercio de bilbao

para el estudio diseño e implementación de una herramienta metodológica

de euskadi en resumen estamos comprometidos con el funcionamiento de los aeropuertos también y en su mejora y para eso utilizamos las herramientas a nuestro alcance dentro del marco competencial que nos corresponde y atendiendo a ese marco competencial y como ya le he señalado anteriormente

en euskadi y en este sentido estamos

en proyectos de gran envergadura por citar algunos de ellos la pasante soterrada del topo en donostia san sebastián o el nuevo tramo entre

las ampliaciones tranviarias de salburua y zabalgana en vitoria gasteiz

la capital gasteiztarra también el cierre

sin olvidarnos del impulso al transporte de mercancías y su conexión a puertos y centros logísticos de las mejoras de la red ferroviaria

y la modernización de las estaciones y por supuesto de la encomienda de gestión que nos habilita para llevar a cabo

y que próximamente como sabe se extenderá a los accesos de bilbao

todos estos proyectos y otros muchos que se encuentran en distintas fases de ejecución y tramitación

sostenibilidad accesibilidad y eficiencia que pone en el centro de la ecuación los derechos de la ciudadanía vasca

y sus necesidades nos queda mucho recorrido

pero el esfuerzo que estamos haciendo es innegable y creo sinceramente señora larrea
que vamos por buen camino muchas gracias eskerrik asko arriola jauna

el programa de detección precoz del cáncer de mama está dirigido a mujeres entre

y permite detectar este tipo de tumores en una fase precoz

mujeres nacidas en el año mil novecientos setenta

no hemos sido llamadas o no han sido llamadas y las que los cumplimos a finales de año de momento no hemos sido llamadas entonces queremos saber cuáles son las en el retraso al llamamiento a las mujeres nacidas en el año mil novecientos setenta para el cribado

fuera del programa de cribado a las mujeres que estaban incluidas en el porque eso es lo que parecía sugerir la justificación de la pregunta

tres meses se cumplirán dos años de la interrupción de la pandemia en nuestras vidas y después de este tiempo no hemos conseguido

social y los servicios de atención sanitaria siguen cuidando de personas infectadas mientras van recuperando el ritmo normal de su actividad

se ha visto retrasada incluidos este y otros cribados ahora estamos

perdido pero no se preocupe el proceso para citar a las personas que han cumplido este año cincuenta años ya está en marcha por ejemplo en araba ya que

las mujeres que nacieron entre mil novecientos setenta y mil novecientos setenta y uno

bueno yo me alegro señora consejera si el objeto de mi pregunta

retraso yo puedo ser comprensiva con la situación derivada de la necesidad

sanitaria pero estamos hablando de un programa muy importante que marca un antes y un después en la detección precoz de este tipo de tumores por cierto

debido al retraso muchas mujeres vascas

detectadas a tiempo con las consecuencias que ello acarrea

que en la medida en que las mujeres nacidas en el año mil novecientos setenta no han sido llamadas al programa

y le quiero recordar que muchas de estas mujeres entre las que me incluyo

el año que viene ya en el dos mil veintidós muchas de estas mujeres van a cumplir o vamos a cumplir cincuenta y dos años y este primer llamamiento se va a juntar con el segundo llamamiento porque como usted bien sabe y conoce obviamente como consejera de salud

es decir creo que esto merece una explicación que el retraso no es tan puntual como usted nos ha hecho ver hoy en su explicación

pero también me reconocerá que es que se está empezando a llamar si ha sido así a las mujeres que han cumplido cincuenta años en el dos mil veinte que son muchas

sucesivamente con lo cual vamos a llevar un retraso significativo

aunque llegue tarde señora consejera de que se retoma el llamamiento a las mujeres nacidas en el año

llamado cómo se va a acelerar el llamamiento y se va a suplir el retraso a las mujeres que ya este año cumplen cincuenta y uno años o han

articular una vez que entre comillas la actividad asistencial programada y no urgente como usted nos ha dicho se ha podido normalizar o reanudar me imagino que ustedes se estarán planteando

recursos adicionales para recuperar el tiempo perdido porque ya le digo estamos ante un programa muy importante estamos hablando de detectar estos tumores

incluso en sobrevivir o no sobrevivir cuando le he recalcado que es uno de los tumores más malignos y más frecuentes entre las mujeres vascas eskerrik asko

en función de su pregunta sino que ya dentro de su organización del cribado

recuperar la normalidad tampoco es como usted explica el llamamiento que se haga con meses los llamamientos normalizados en los cribados llevan otro tipo de organización priorizando en función también de otros elementos esos grupos de mujeres que pueden tener mayor riesgo e incidencia por antecedentes familiares por ejemplo de ser posibles

y así se hizo porque se priorizó el envío de citas a las mujeres pendientes de controles intermedios a seis y doce meses que ya habían sido llamadas anteriormente siguiendo con el plazo establecido para ello

familiares importantes para poder priorizar su análisis además además

la apertura de nuevos turnos de trabajo por las tardes y los sábados la optimización del sistema de citación

hasta completar su último estudio porque había algunas que habían completado el último

como lo explicamos en la presentación de los presupuestos y en la que vamos a invertir cuatro coma nueve millónes de euros en la renovación de los mamógrafos mamógrafos con nuevas técnicas

hemos perdido unos meses de trabajo como hemos perdido unos meses en muchos de nuestros aspectos de nuestra vida pero le aseguro que los estamos recuperando de una manera
rápida y además lo vamos a hacer con aun mayor precisión eskerrik asko eskerrik asko

el lunes comenzaremos a facilitar citas a las personas mayores de sesenta años para administrar la dosis de refuerzo o tercera dosis para eso utilizaremos la web de osakidetza y la llamada a los centros de salud unas de las medidas

y con respecto a los menores de entre cinco y doce años no se sabe aún la fecha ni la cantidad de vacuna que llegará porque la compra se hace para toda la unión europea como saben y dependemos de la disponibilidad de los laboratorios que la fabrican y por otra parte los órganos del consejo interterritorial aún no han abordado la estrategia para llevar a cabo esa vacunación sin duda una de las principales herramientas

la misma inquietud y tenemos esa preocupación

teknologien erabilera segurua izan dezaten sustatzen usted me preguntaba qué medidas va a adoptar el gobierno vasco y qué es lo que estamos haciendo

guía pedagógica para trabajar la educación en las nuevas tecnologías esta guía promovía el uso responsable preventivo y educativo de las nuevas tecnologías y estaba dirigida

en el año dos mil dieciséis se trabajó y publicó otra guía dirigida esta vez a padres y a madres su objetivo era capacitarnos

vasca del deporte con las direcciones de deportes y con las tres diputaciones forales y se elaboró una tercera guía dirigida a los entornos deportivos

organizamos un concurso anual en el que los grupos de menores realizan una reflexión crítica y constructiva sobre su uso y el uso de las nuevas tecnologías digitales con el trabajo de reflexión se dan forma a

y todos esos materiales como usted ha dicho y esa información puede consultarse en el espacio de la web del servicio zeuk esan el ciento dieciséis mil ciento once

atenderemos y atendemos a menores que ya están viviendo una situación complicada por un uso inadecuado de las nuevas tecnologías argi daukagu internetek aukera

eta sare sozialek protagonismo handiagoa hartzen baitute la tecnología es cada vez más asequible y además sigue evolucionando vertiginosamente y cualquier persona podemos acceder a internet mediante nuestro teléfono móvil

con acceso a internet continúa además bajando prestakuntza eta informazio gehiago behar da bai ikastetxeetatik eta bai gurasoetatik y se necesitan

hemos trabajado y estamos trabajando con familias con personas expertas con profesorado con entidades vinculadas a la infancia compartiendo una reflexión común partimos de la base de que los espacios digitales y tecnológicos

porque cuando nuestros hijos e hijas juegan en la calle en el barrio o en la plaza

gabe y sabemos transmitir estos cuidados porque también los recibimos de nuestros padres

con las nuevas tecnologías nuestros hijos e hijas también necesitan ese mismo acompañamiento y se puede optar por una restricción total del uso

una alternativa puede estar basada en la educación más autoritaria

extremo puede estar basada en una educación demasiado permisiva la decisión está en las familias y casi siempre en el punto medio suele estar la virtud tenemos que enseñarles a tener su propia autonomía eso también usted lo decía los términos intermedios son la clave para una mejora experiencia educativa

ikasteko aukera izan dezaten con las guías del gobierno lo que estamos haciendo o el gobierno lo que está buscando es que exista un acompañamiento seguro y libre para que las personas jóvenes puedan explorar y aprender

segura estos materiales tratan de dejar algunas ideas claras sobre los riesgos que existen tras estas herramientas digitales y la manera de usarlas de una forma segura

para vivir experiencias positivas y compartirlas usted lo decía

o sexting son términos que desgraciadamente escuchamos cada día más y no son exclusivos de euskadi sino son fenómenos globales

los peligros los riesgos entre los que navegan nuestros hijos e hijas cuando se adentran en los espacios digitales y tenemos que advertirles y prepararles para reconocer y

informar formar capacitar a menores y familias y agentes educativos es clave como usted decía para acompañar a caminar en positivo en el uso que hacemos de las tecnologías

las tecnologías digitales evolucionan de manera muy rápida y tenemos que prestar nuestra atención para detectar esos nuevos riesgos tenemos que adecuar permanentemente nuestros contenidos para hacer frente a los cambiantes peligros de las redes sociales

estamos trabajando además por rangos de edad y estamos preparando nuevas guías desde el nacimiento o la primera infancia hasta la adolescencia

en la publicación a primeros del año dos mil veintidós de nuevas guías actualizadas para familias

y el uso de las redes sociales consejos para cuidar las primeras relaciones entre los niños y niñas y las nuevas tecnologías en tercer lugar hacer un análisis de las diferentes redes sociales y aplicaciones que pueden darse

en función de las edades de los niños niñas y adolescentes conocer las pautas de seguridad para el uso de estas nuevas tecnologías información en el apartado legal

desde una perspectiva positiva educativa y práctica y nuestras guías lo que pretenden ser es que sirvan a las familias para adquirir esas habilidades esas capacidades digitales que puedan implementar en la crianza de sus hijos e hijas

creo que una involucración desde hace ya muchos años frente a los riesgos

erabiltzeko eskubidea jasoko dugu la futura ley como le decía impulsará también iniciativas de sensibilización y concienciación

y atención a trastornos de salud mental conductas problemáticas y adicciones y como usted sabe también estamos trabajando en la elaboración de una y además de forma participativa de la estrategia vasca contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia

los problemas que pueden derivar de un uso inadecuado de las tecnologías digitales por tanto trasladarle señora martinez

que el gobierno también lo tiene que ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo

serán bienvenidas porque creo que tenemos todos un mismo fin como le decía

hacer un uso adecuado de una herramienta que nos viene para ayudar y que creo que además

pero sí que es verdad que tiene esos riesgos que tenemos que tener en cuenta para atajar

y su seguridad por lo tanto tiene que ver con las intenciones con las necesidades con los gustos con las reacciones y también con las formas de entender

más o menos como lo que pasa en la vida misma así que preguntarnos si las nuevas tecnologías son seguras

tiene muchas interacciones continuamente estamos interaccionando entre las personas y para bien o para mal

surgen situaciones que tenemos que ajustar y que tenemos que controlar o que tenemos que

daño a nosotros mismos internet en ese sentido es un buen espejo de lo que pasa en la vida

si queremos proteger a nuestros hijos e hijas debemos preguntarnos por lo menos desde mi punto de vista cómo preparamos a nuestros hijos e hijas para esa nueva vida para ese uso de esa nueva herramienta y en el informe de unicef que usted mencionaba según los datos que se analizaban

la atención la poca supervisión que ejercen los padres y las madres

y esto puede ser porque las familias no seamos conscientes o no sean conscientes de la labor de acompañamiento que necesitan esos hijos e hijas o porque no sepan cómo hacerlo porque a veces también es verdad que no lo saben como en cualquier ámbito solo podemos movernos con seguridad y confianza si conocemos las herramientas que utilizamos

cuánto más avanzamos en su conocimiento con más seguridad abriremos las puertas para que nos encontremos en el camino adecuado y desde esta perspectiva es

las iniciativas que hemos desarrollado y estamos desarrollando son un claro ejemplo de ellos le decía la futura ley la ley de infancia va a contemplar esa cuestión porque para nosotros es relevante la estrategia de la violencia contra la familia contra la familia no hacia el quinto plan de apoyo a las familias el servicio zeuk esan

durante la pandemia pusimos en marcha este programa que tenía como objeto

a que pudieran llevar a cabo esas tareas en sus casas cuando estaban confinados sino también era un servicio y ha sido un servicio útil para que sus familias adquiriesen esas competencias digitales para acompañar en las tecnologías digitales a sus hijos

y el apoyo necesario para ejercer esa labor educativa y como ve yo creo que estamos y seguimos en esa tarea habla usted del sistema educativo y que también

y también que creo que estamos trabajando en esa línea instan a que las instituciones dispongamos de medidas de mecanismos de protección y bueno yo creo que la ley que en el año dos mil veintitrés

va a ser una estrategia fundamental estamos totalmente alineados en la que es las recomendaciones que realiza unicef y yo de verdad creo que

desde su grupo esas aportaciones que nos puedan hacer llegar para mejorar en una cuestión tan importante y relevante se plasmen en esas enmiendas que en el futuro puedan trasladarnos